presentamos una iniciativa parlamentaria para instar al gobierno vasco a presentar en este parlamento un proyecto de ley de transparencia que recogiera una serie de principios doce que nosotros consideramos fundamentales en concreto los siguientes

el derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas a todos los poderes del estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas

el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada recibida o en posesión de las entidades públicas sin importar cómo esté almacenada realizar solicitudes debe ser sencillo rápido y gratuito los funcionarios tienen la obligación a los solicitantes el secreto y la denegación de la información son la excepción la denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional

limitadas y estar debidamente motivadas toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas las entidades públicas a iniciativa propia deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario

una solicitud el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente el gobierno a través de sus instituciones será el principal encargado de realizar labores de promoción del derecho y de las nuevas herramientas proporcionadas por la ley último principio que consideramos fundamental se establecerá en la ley sanciones en relación a las infracciones que se cometan

e independiente una ley diferenciada del resto de la legislación vasca y en concreto

y disciplinar el quehacer de la administración pública vasca una ley de transparencia avanzada de tal nombre una ley que facilitara a los ciudadanos el conocimiento de toda la información de la que disponen las distintas instituciones y que fuera más allá que la ley nacional que ya criticamos en el congreso de los diputados por ser claramente insuficiente en la justificación de aquella iniciativa decíamos que

acceder a toda aquella información que les permita conocer y evaluar con objetividad la actividad de las diferentes instituciones públicas tal información debe considerarse como de los ciudadanos que las administraciones públicas y el sector público han de generar de manera activa la información relevante para la comprensión de su actividad y deban hacerla

a los ciudadanos que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad la eficacia la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas contribuyendo así a reforzar su legitimidad toda información registrada de cualquier forma

es pública que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso darán a la misma y tienen el derecho a recibir una respuesta en un plazo breve

y comprensible que las medidas para la mejora de la transparencia de la gestión pública son particularmente eficaces en periodos

o económica o en periodos de desconfianza ciudadana en las instituciones como es el nuestro pues inducen un mejor y más eficaz funcionamiento de las instituciones políticas

al introducir principios de evaluación y seguimiento público del resultado de las decisiones administrativas que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación hoy poner en práctica sistemas de acceso público a la información impensables hace solo unos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de excusa para no activar toda esa información

que cualquier entidad o persona que se beneficie de ayudas públicas debe dar cuenta igualmente pública del uso de esas ayudas y someter su actividad a auditoría externa

con especial énfasis en la lucha contra la corrupción el despilfarro y la mala gestión

para lograr estos objetivos hay además que reformar las instituciones públicas y privadas más implicadas en su desarrollo es decir aquellas instituciones que ofrecen

despilfarro y corrupción que las actividades o que las políticas activas de transparencia también tienen importantes y positivas consecuencias de índole y financiera y a partir de ahí presentábamos nuestra iniciativa para instar al gobierno a presentar en el plazo máximo de seis meses decíamos un proyecto de ley de transparencia que se rija por el principio democrático según el cual el derecho de los ciudadanos está

y que tenga en cuenta y corrija las limitaciones de la recientemente aprobada ley nacional de transparencia esta ley de transparencia pedíamos deberá respetar y cumplir

he señalado también proponíamos que este parlamento instara al gobierno al desarrollo de un portal de transparencia que dé cabida a toda la información relativa a la administración donde como mínimo pudieran quedar reflejados las retribuciones e indemnizaciones por razónde servicio de los cargos electos altos cargos y miembros del gobierno el registro de actividades bienes e intereses de los cargos electos altos cargos y miembros del gobierno

pública vasca las listas de contratación temporal del personal los expedientes de gasto que no tengan conformidad de la intervención y que deban ser convalidados por elconsejo de gobierno las concesiones administrativas los convenios de colaboración y el régimen subvencional de la administración del gobierno vasco

las resoluciones administrativas y judiciales la información que sea solicitada con mayor frecuencia y el gasto público realizado en campañas institucionales y sus

un buen cúmulo de exigencias avanzadas al actual gobierno

habría que incluir en ese portal de transparencia un registro de contratos un registro de adjudicatarios un registro de convenios de colaboración y un registro subvenciones partíamos del principio de que toda información registrada de cualquier forma elaborada o recibida y en posesión de las autoridades es pública de modo que tiene que ser accesible

otro derecho legítimo que pueda prevalecer sobre el derecho a la información por decirlo claramente la información de la que disponen las instituciones es

y legitiman su actuación es bueno por lo tanto para ellas y para todos

inducen un funcionamiento más eficaz de las propias instituciones una política transparente propicia que se limiten

con lo que también se conseguirá que se dificulten al máximo las prácticas que favorecen la corrupción el clientelismo la mala gestión el enchufismo o el despilfarro

el gobierno vasco decidió presentar finalmente su proyecto de ley de la administración pública vasca donde se incluyeron los asuntos relacionados con la participación la transparencia a la información analizada aquel proyecto de ley ya dijimos en su momento que era un proyecto de ley que se quedaba corto y se quedaba muy lejos de los principios que defendemos y que en su día ya defendimos también en este parlamento de ahí que presentáramos una buena batería de enmiendas parciales y también la correspondiente enmienda de totalidad

de la ley nacional de transparencia una ley que ya en su momento criticamos por insuficiente al tomar como modelo una ley que no supo adaptarse

el gobierno vasco nacía muy limitado partía de la ley nacional y no

además el proyecto no preveía un régimen de sanciones jurídicas en caso de incumplimientos o que la transparencia no sea un derecho absoluto pero es que además la primera parte del proyecto de ley que nos trajo el gobierno aquella que hacía referencia a la organización de las administración pública vasca también era francamente

que simplificara su entramado que redujera y acotara su maraña de entes y sociedades se limitaba a hacer una enumeración de las distintas tipologías de órganos administrativos difícilmente se podrá mejorar la percepción de la ciudadanía respeto a la llamada cosa pública su revalorización

de una nueva cultura administrativa según se reflejaba en la introducción si lo que se regula no intenta simplificar clarificar reducir y modernizar entramado institucional vasco se limitaba a enumerar las distintas tipologías de entes y órganos y como crear otros nuevos como si no hubiera suficientes en la actualidad

se seguía apostando por un modelo complejo el gobierno nos trajo por lo tanto un proyecto de ley farragoso que no daba ningún paso adelante en ese campo

y la disolución fusión absorción de los que se consideren innecesarios introduciendo un horizonte temporal para llevar a cabo esas operaciones

si quiera una estrategia de simplificación y reducción del entramado administrativo o de control de las externalizaciones o de las encomiendas

en fin no queremos echar demasiado la vista atrás pero lo cierto es que el gobierno vasco utilizó su capacidad legislativa como acción propagandística y cosmética se negó permanentemente a dialogar a negociar

lo que tuvo que hacer lo que decidió hacer libremente fue retirar ese proyecto de ley de administración pública fue ciertamente curioso escuchar al portavoz del gobierno decir que

un buen número de enmiendas parciales planteadas por los diferentes grupos llegó a hablar de más de trescientos enmiendas parciales que el gobierno estaba dispuesto a aceptar pero ya fuera de plazo cuando ya

de hacer una buena ley no hubo voluntad de hablar con el resto de grupos no hubo voluntad creo yo de aprobar esa ley y definitivamente se retiró

que es absolutamente indispensable que euskadi tenga una ley de transparencia diferenciada de lo que sería la ley referida a la administración pública de ahí

nosotros hemos presentado y que defiende básicamente eso presentar antes del treinta de septiembre de dos mil quince dos proyectos de ley uno sobre transparencia

de la administración pública separados e independientes que cumplan los principios fundamentales que ha defendido upyd en relación a esta cuestión

otros grupos que tenga en cuenta esas enmiendas parciales que el resto de grupos presentamos para que esa ley pueda ser lo más avanzada posible y pueda ser

pedimos también al gobierno que en el proyecto de administración pública se incluya la regulación y ordenación del sector público de todas las administraciones que operan en euskadi la general la foral y la local en fin

transaccional creo si no me equivoco entre eh bildu grupo socialista y grupo nacionalistas vascos creo que está bien recogido lo que nosotros pretendíamos creo que es una buena transaccional y por lo tanto nosotros

transaccional se cumpla el gobierno vasco haga su trabajo y tengamos cuanto antes esos dos proyectos de ley dos proyectos que son muy importantes para los ciudadanos vascos seguramente los dos pero queremos resaltar la importancia que tendría la aprobación de una ley de transparencia avanzada

que tenga en cuenta el tiempo que vivimos y que vaya mucho más allá de lo que va la ley nacional aprobada en su momento por el gobierno de españa